en la actualidad el término gobernanza se ha constituido como pieza esencial y exigencia obligada para todas las administraciones públicas que quieren responder a las demandas de la ciudadanía desde la eficiencia y eficacia

lo público sabemos que el gobierno vasco es consciente de la importancia de una buena gobernanza que tiene un compromiso firme en ello y de ahí

en la gobernanza pública conocemos tal y como usted manifestó en el acto público celebrado el viernes pasado veintisiete de octubre que el plan estratégico de gobernanza e innovación pública dos mil veinte se encuentra en una fase avanzada de elaboración

a falta todavía de los últimos retazos se puede ya adelantar

más amplia en este formato que los objetivos estratégicos del plan estratégico de gobernanza e innovación pública dos mil veinte son cuatro uno una administración

que refuerza las políticas de integridad institucional promueve la transparencia y participación e impulsa la planificación estratégica y elaboración dos una administración eficaz que ofrece servicios de calidad y profundiza en los servicios electrónicos mejorando ostensiblemente su accesibilidad y su usabilidad

una administración eficiente que sustituya progresivamente el modelo burocrático clásico ya superado por un modelo nuevo de gestión pública avanzada adaptando y adecuando sus estructuras organizativas

de las personas en la organización con arreglo al nuevo modelo y cuatro una administración innovadora innovadora que implique a la ciudadanía y también a los profesionales de la administración en el diseño en la gestión y por supuesto también en la evaluación de los servicios públicos

pero las normas pueden contribuir decisivamente a impulsar el cambio o a que el cambio definido o proyectado se produzca de manera efectiva y me interesa mucho hacer notar este punto porque una vez aprobado el plan estratégico de gobernanza e innovación publica que traeremos a la cámara a principios del año que viene sus previsiones evidentemente se aplicarán

si se aprueban las dos iniciativas que han sido ya registradas en la cámara por los grupos parlamentarios nacionalistas vascos y socialistas vascos sobre el sector público y la transparencia y la participación su rápida tramitación que solicito a todos los grupos de la cámara

para que puedan convertirse en realidad los objetivos de este nuevo modelo de administración pública por el que apuesta el plan estratégico de gobernanza e innovación publica

dónde queda la ponencia de autogobierno señor arriola vosotros

limitaciones acordes a vuestro ideario político eso es chantaje aunque como ideología política tenga otro nombre

de la necesidad de reconocimiento y respeto a la realidad nacional de euskadi

pero a la vez uno de los principales impulsores del ciento cincuenta y cinco de la intervención de la autonomía catalana del encarcelamiento de todo un govern nos preguntamos

a dar cauce esa demanda que es mayoritaria entre la ciudadanía vasca

nos preguntamos dónde pueden quedar los derechos de este pueblo cuando hay un socio en el gobierno que defiende el ciento cincuenta y cinco es decir la intervención de una autonomía como la nuestra o la implantación de un estado de excepción en caso de que la ciudadanía no vaya acorde a las posiciones políticas de pp

pero sabe usted perfectamente que este supuesto de derecho no aparece recogido en ninguna constitución ni convenio internacional porque es una expresión cosmética para referirse a la autodeterminación como medio para conseguir la independencia

ustedes en euskadi el derecho a decidir o la autodeterminación precisamente para eso

de españa o no pues bien si usted va al último sociómetro del gobierno vasco verá que

no precisamente una mayoría de la ciudadanía de este país

al gusto y en cuanto a si es compatible la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en cataluña con el hecho de que el pse euskadiko ezkerra psoe esté en el gobierno de las principales instituciones del país vasco ya ve usted que lo es acaso no me está usted preguntado

y le diré más no solo es compatible sino que es bueno para este país porque la presencia de los socialistas en el gobierno vasco no solo ofrece a euskadi estabilidad y certidumbre sino que ayuda a que nos dediquemos a atender

de forma intensa y mayoritaria trabajar para reducir las cifras de paro y crear empleo reforzar nuestra sanidad trabajar también

para apostar por innovación por la educación porque el sistema de protección social

en definitiva por las cuestiones que preocupan realmente en el día a día a la ciudadanía vasca y junto a todo ello y no menos importante para garantizar el respeto y la convivencia plural de la ciudadanía vasca porque si españa es diversa

es la propia euskadi eskerrik asko

reivindica el derecho a decidir y por otra parte dice que nunca apoyaremos el derecho a decidir porque no es democrático por boca de su secretaria general pues no va ningún lado y este gobierno no camina hacia ningún lado decís que el ciento cincuenta y cinco fuera queda fuera del acuerdo del gobierno y nos preguntamos para

no lo es la intervención de una autonomía no lo es la posibilidad de encarcelar un gobierno elegido democráticamente en las urnas quisiéramos una respuesta al respecto

no es un gobierno viable no es un gobierno viable pero tampoco es ético

que va en contra de las aspiraciones que son mayoritarias en la sociedad por eso décimos que el partido socialista de euskadi

a este pueblo y ser parte del gobierno porque este pueblo mayoritariamente demanda poder decidir y que su decisión sea respetada creemos sinceramente

en este programa lo que viene recogido literalmente es que apostamos por la reforma del autogobierno

tramitada de acuerdo con las normas y procedimientos legales vigentes con un propósito y el propósito es profundizar en la convivencia democrática

y la justicia social ese es el propósito de la reforma y mejora del autogobierno desde luego el propósito no es dividir a la sociedad y conseguir los resultados que estamos viendo hoy en día en cataluña parece que usted lo quieren evitar

el ejemplo que está ocurriendo en cataluña y desde luego no

me hable usted de ética que me dé lecciones de ética a mí

lecciones de éticas de ustedes ninguna ninguna para nosotros en todo caso si quieren ustedes volver a aprender mucho de las lecciones que podríamos darles los socialistas

y aquí estamos en pie como siempre sosteniendo nuestras ideas

usted sabe perfectamente que el partido socialista ha sido de los que más han trabajado para intentar evitar que se aplicara el ciento cincuenta y cinco y si se ha aplicado

y su gobierno han despreciado todas las oportunidades que han tenido encima de la mesa

cuando ni siquiera puigdemont y el propio junqueras lo están haciendo en estos momentos afectando como están afectando las elecciones

si la propuesta de bildu es imitar el ejemplo de cataluña y llevarnos al desastre desde luego no cuenten ustedes

el mayor presupuesto con el que ha contado nunca el gobierno vasco el mayor presupuesto de la historia sin embargo puede hablarse del mayor presupuesto de toda la historia cuando en educación no alcanzamos las cifras del dos mil diez mila esker

ni el contexto presupuestario de estabilidad y sostenibilidad financiera hace que sea comparable con la situación del año dos mil diez que usted pretende comparar

y sabe cómo se mide esto fijándonos en la inversión más que en el gasto corriente o en el monto total pero aun así

cuando el conjunto del presupuesto es de un tres coma nueve por ciento pero sobre todo sabe cómo se mide si este es un buen presupuesto en educación

lo que se invierte y de nuevo el presupuesto que han reservado es de vergüenza

una imagen vale más que mil palabras para este año se ve claramente que no se alcanza ni siquiera la inversión del dos mil diez ni qué hablar de recuperar el nivel de inversión de años anteriores a la crisis para dos mil dieciocho ustedes han presupuestado dos mil setecientos diecisiete millónes de euros en inversión en educación

los datos hablan por sí solos tenemos un presupuesto que invierte ciento treinta millónes menos que en dos mil ocho es decir que antes de la crisis

hori ere larria bada ere zertan inbertitzen den baizik desde elkarrekin podemos lo repetimos en numerosas ocasiones

y en qué y lo realmente preocupante de los presupuestos que ustedes han presentado para educación

que han aumentado respecto al año anterior es y cito literalmente para impulsar la mejora de la educación a través de la expansión de los conciertos educativos y nosotros nos preguntamos de verdad este gobierno cree que hay mejor forma de mejorar el sistema educativo que no pase por mejorar la financiación de la educación pública

de verdad cree este gobierno cuando hay manifestaciones y protestas de padres y madres

públicos y se da más dinero a la red concertada gure apustua argia da sare publikoa indartzea reforzar la red pública la única herramienta válida para garantizar la igualdad de oportunidades y compensar las diferencias que día a día se evidencian en las escuelas vascas

caer la cara de vergüenza señora uriarte por seguir dejando

por dejar de lado las demandas de padres y madres para mejorar la escuela pública

por desatender las reivindicaciones de sindicatos y trabajadores de la enseñanza pública que están movilizándose hoy mismo hoy viernes de verdad cree que tiene algo

señora macazaga tal y como le he trasladado en mi primera intervención ambos presupuestos no son comparables los presupuestos de la comunidad autónoma de euskadi para dos mil diez se enmarcaron en un contexto de recesión económica profunda y más duradera de lo previsto

hasta que el contexto económico ha ido mejorando ha sido necesario recurrir al endeudamiento pasando de un nivel de deuda de doscientos cuarenta y cinco millónes en dos mil diez

utilizando su propia argumentación y si comparamos la inversión con años atrás descontando la deuda el proyecto de presupuestos del dos mil dieciocho representa dos mil setecientos dieciséis coma ocho millónes el veintiséis coma setenta y nueve por ciento del total frente a los dos mil seiscientos treinta y cuatro coma ochenta y nueve millónes y veinticinco coma cuarenta y cinco por ciento del total en el ejercicio dos mil nueve

señora san josé usted como consejera de trabajo y justicia del gobierno vasco conoce perfectamente que las instituciones europeas llevan tiempo

europeo de derechos sociales que sirva de guía de actuación de los países de la unión

anunció en el discurso que hizo en la sección de debate sobre el estado de la unión europea

sociales a partir de este momento la comisión europea elaboró un primer esquema

pública el diecinueve de enero de este año el parlamento vasco aprobó una resolución presentada por la

posteriormente el veintiséis de abril la comisión europea adoptó una recomendación sobre el pilar europeo de derechos sociales

y en veinte principios fundamentales por fin el pasado veintinueve de octubre los ministros de empleo y asuntos sociales de la unión europea por unanimidad han dado

esta declaración de compromiso político debe ser ratificada en la cumbre social para el empleo justo y el crecimiento que se celebrará el próximo diecisiete de este mes

a esta cumbre asistirán los jefes de estado y el gobierno de los países de la unión europea además de representantes de diferentes organizaciones sindicales empresariales y sociales un escenario de la mayor importancia para certificar el pilar de derechos sociales que tiene como objetivo

cohesión social en la unión europea estamos ante un compromiso político de naturaleza social y laboral se pretende avanzar en la adaptación de un modelo social actual a los nuevos retos que nos encontramos en la primera parte del siglo veintiuno

en este dilatado debate que se ha desarrollado a nivel de las instituciones y organizaciones sociales europeas se han hecho hincapié en la necesidad de crear empleo de calidad es significativo que esa resolución del parlamento europeo a la que

es esencial que las empresas tengan un comportamiento responsable desde el punto de vista social y tengan realmente presentes la sostenibilidad y los intereses de la sociedad resulta útil involucrar a los trabajadores en las tomas de decisiones

ofrecen un buen ejemplo a la hora de crear empleo de calidad apoyar la inclusión social y fomentar la economía participativa señora san josé entre sus funciones diarias y actuación del departamento de trabajo y justicia se encuentra la economía social

laborales y economía solidaria la resolución del parlamento europeo relaciona directamente la economía social con el desarrollo de los objetivos del pilar europeo de derechos sociales es indudable el valor que tiene el sector de economía social en nuestra comunidad autónoma por su historia consolidación

como consejera del gobierno vasco responsable del área de economía social le quiero preguntar en concreto señora san josé qué puede aportar la experiencia vasca en materia de economía social al desarrollo

señora sánchez realmente me plantea usted una cuestión de gran interés y actualidad

anunciarle a usted y a toda la cámara que a mediados de noviembre dentro del marco de la próxima cumbre europea de gotemburgo vamos a participar

el papel de la economía social en el futuro del empleo conferencia internacional

y cuyas conclusiones serán trasladadas a la cumbre de jefes de estado de la unión europea que al día siguiente tiene previsto aprobar el denominado pilar europeo de derechos sociales

de promover el bienestar y el desarrollo sostenible con tres vertientes principales igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo condiciones de trabajo justas y protección e inclusión social a la conferencia

fue invitado el lehendakari a presentar la importancia de la economía social en el país vasco

y sinceramente creo que no es casualidad que entre todas las regiones europeas haya sido la comunidad autónoma vasca la seleccionada para hablar de la realidad de su economía social

la economía social está considerada por las instituciones europeas como uno de los pilares del modelo social europeo

de septiembre del dos mil seis sobre un modelo social y concretamente en la resolución del dos mil nueve sobre economía social se vuelve a remarcar el papel de la misma

social en el conjunto de la economía europea por conjugar rentabilidad

crear empleos de calidad reforzar la cohesión económica social y territorial generar capital social y promover una ciudadanía activa y solidaria una forma de economía dotada de valores democráticos que sitúa al ser humano en primer plano y contribuye al desarrollo sostenible y a la innovación social

institucionales y de la economía social europea para abordar el desarrollo de la misma y contribuir al diseño de la estrategia conjunta de la unión europea a favor de este modelo de empresa entre las medidas que se están poniendo en marcha y que van a seguir implementándose en los próximos meses

el acceso de la economía social a la financiación y a los mercados y la de mejorar los marcos normativos y son estas las cuestiones que estamos tratando aquí juntamente con el sector y que se verán reflejadas en el anteproyecto de ley de cooperativas que estamos elaborando

para poner en valor la economía social vasca y una gran oportunidad para explicar

estamos alineados con esa idea que tiene europa y nuestra experiencia es un ejemplo para el conjunto de la unión el compromiso del gobierno vasco con la economía social es y voy a gotemburgo con el objetivo de dar a conocer una realidad muy positiva de país es mi voluntad vender euskadi y apoyarme en ello y tenemos datos que nos avalan

que expondré con más precisión el día dieciséis el ecosistema de la economía

en su mayoría cooperativas y sociedades laborales el empleo total supera las

y durante la crisis a pesar de algunas dificultades la caída del empleo fue de hasta seis puntos inferior a la del resto de empresas besterik ez eskerrik asko

gracias buenos días señores consejeros señorías señor erkoreka
qué criterios ha guiado la lección de quebec como destino de viaje de una delegación institucional encabezada por el lehendakari

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor alonso me pregunta por los criterios

dos mil veinte aprobada por el gobierno vasco el pasado ocho de abril y que tiene como objetivo se lo leo

global con un espacio propio en la construcción europea un país atractivo altamente competitivo

y estrechamente conectado con la comunidad vasca en el exterior es la propia estrategia de internacionalización que lleva en vigor varios meses la que identifica precisamente a quebec como socio prioritario por euskadi

y aparece en todos los medios de comunicación haya estado repleta de actos de contenido económico cultural tecnológico y medioambiental además por supuesto haber incluido contactos de tipo político e institucional que nunca pueden faltar en este tipo de viajes

con la comunidad vasca quebec se incorpora así a la red de alianzas estratégicas de euskadi que junto con otras seis regiones líderes mundiales de diferentes continentes de europa américa y asia como aquitania baviera flandes querétaro jiantsu cundinamarca

es un viaje repleto de oportunidades de tipo económico que puede situar a ambos frentes al quebecua y al vasco como puertas de entrada
en la fachada atlántica de ambos continentes tiene ofrece muchas posibilidades desde el punto de vista económico eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

le agradezco la respuesta señor consejero es verdad que su respuesta no parece tener mucho que ver con las informaciones que vamos recibiendo de cómo se va desarrollando

y también es verdad pues que no figura

los principales destinos de las exportaciones de nuestras empresas o nuestros principales socios comerciales creo que hace el número treinta y uno

económica y sí parece una razón política elegida desde nuestro punto de vista y he decírselo de forma inoportuna dado el contexto político

en el que vivimos ahora mismo en españa y también en el plano internacional

el momento elegido para visitar quebec creo que no ayuda a sembrar certidumbre y que no ayuda tampoco a hacer de euskadi un lugar más atractivo que es el objetivo que dicen

de viajes nosotros en todo caso esperamos que ya que ha ido el lehendakari allí pues aprenda porque viajando se aprende mucho antes decían que viajando se curaba el nacionalismo

a crear problemas a dividir las sociedades a generar incertidumbres

añadidas pues problemas económicos como los que vemos en cataluña donde las empresas se van esto ocurrió en quebec

también por un impulso independentista un periodo de incertidumbre que tuvo consecuencias muy graves para su sociedad consecuencias graves para la economía

pero que no ha vuelto ninguna no han vuelto las empresas que se marcharon en su día de quebec porque era un lugar inestable no han vuelto allí le habrán contado que también la población se marchó

desde entonces desde que empezó con ese impulso independentista

la región más subsidiada de canadá y que porque es ahora mismo la más pobre la que menos

fue la capital financiera de canadá todo eso queda lejos habrá sacado la lección

no lleva a ninguna parte interesante para el desarrollo social y el desarrollo económico no tenía que haberse ido tan lejos para aprender eso pero nosotros esperamos que al menos haya aprendido eso en el viaje

ustedes presentaron una reforma financiera aprovecharon que no estaba el lehendakari si hubiera una reforma fiscal si hubiera salido bien pues habría habido rueda de prensa en lehendakaritza como salía mal pues se hizo en víspera de festivo y con el lehendakari fuera

nosotros entendemos que hay que colaborar que hay que ayudar que hay que buscar la estabilidad

pero yo creo que es muy importante cumplir los compromisos que tenemos adquiridos y los acuerdos a los que hemos llegado vamos a trabajar para que se pueda enmendar y que podamos

y vamos a seguir trabajando para demostrar una cosa que a través del acuerdo entre que representan las diferentes identidades aquí en euskadi cuidando la convivencia a través de la negociación entre gobiernos y entre partidos es donde podemos sacar un fruto positivo

que aleje de incertidumbres en euskadi que no nos haga seguir malos ejemplos y que por tanto pueda conseguir lo que usted decía que tienen como objetivo en su agenda que es hacer
de euskadi un territorio verdaderamente atractivo muchas gracias eskerrik asko alonso jauna erkoreka jauna zurea da hitza

para comprender el sentido del viaje y darse cuenta de que es cualquier cosa menos improvisado o condicionado por la coyuntura política fíjese este viaje empieza a esbozarse hace cuatro años con ocasión de una visita que entonces cursó a quebec la entonces consejera de medio ambiente y política territorial del gobierno vasco ana oregi y el lehendakari

en la cumbre del clima del país en diciembre del año dos mil quince si quiere una referencia temporal puigdemont ni tan siquiera había sido elegido presidente en aquel momento y dicho esto su pregunta me suscita tres reflexiones primero

en vender la imagen del lehendakari como un radical peligroso e irresponsable

segundo ha consultado usted con el ministerio de exteriores este empeño en denostar y descalificar quebec y canadá en general como destino de la acción exterior de las comunidades autónomas consúltelo por favor porque yo veo

o en presentar a canadá como un país socio y amigo y en tercer lugar me habla usted de aprender que el lehendakari va aprender allí pues sí mire fíjese es que canadá tiene mucho que enseñar a euskadi

ha sido capaz de dar cauce a conflictos territoriales en clave estrictamente democrática y no en clave cómo le voy a decir yo no desde los presupuestos

que eso sí que no encauza a ninguna parte y eso sí que no que impide todo acuerdo y todo entendimiento

ha formulado una propuesta que descansa sobre cuatro pilares diálogo permanente principio democrático principio de legalidad y negociación y bilateralidad tanto daño les hace a ustedes estas palabras tanto le preocupan estos principios

la única violencia que he visto la verdad estaba envuelta en una bandera española esa es la única violencia violencia fascista que he visto en cataluña

visto lo visto el estado español nunca defrauda la gente

previsible y recuerdo que le conté a jordi turull portavoz de la generalitat ahora encarcelado

más me llamó la atención cuando entré en el grupo de euskal herria bildu era cuántas

habían pasado por la cárcel por defender ideas políticas solo por eso por hacer política
mesedez isiltasuna y además hoy no es vuestro día

el ciento cincuenta y cinco por tanto dejarme hablar no es más y le expliqué que ya la cárcel ya es parte de nuestra cultura y que a veces por ejemplo salimos al patio de aquí del parlamento y décimos vamos a dar un paseo carcelario de esos de izquierda derecha de pocos metros y

patrimonio cultural y material vasco ha entrado en nuestras vidas y es además por cortesía del estado español eta orain turull

dago ideia horiek modu baketsuan defenditzearren kartzelan dago por eso voy a recoger las palabras del propio turull que ha escrito

les dice que no se preocupen por él que está bien porque está convencido

de que lo que ha hecho no es ningún delito ni le hace mal a nadie

al pueblo de cataluña sabemos mejor que nadie lo que estáis sufriendo y lo que os queda por sufrir lamentablemente pero está bien está bien lo que estáis

orgullo porque es una lección de dignidad lo que estáis dando al mundo eso es lo que queremos decir a cataluña

los del ciento cincuenta y cinco cuanta mentira cuanta mentira

una idea legítima la independencia como se ha defendido en otros países de europa pero la respuesta del estado ha sido la española primero golpes y luego cárcel

del estado un estado que no persigue delitos un estado que persigue ideas ya lo ha avisado además el vicepresidente del senado el señor pedro sanz si el veintiuno de diciembre ganan los independentistas

lo de españa creo que es además un problema cultural un problema cultural con el no no acepta la disidencia política es además un problema cultural que viene de lejos de hace siglos

además hoy en día por ejemplo se repiten los mismos parámetros que durante la inquisición con una diferencia entonces

en nombre de dios y con una cruz en la mano ahora se persigue en nombre de la ley y con la constitución en la mano ahora sí ha habido una pequeña diferencia antes se quemaba a la gente en la hoguera y ahora afortunadamente solo se le mete a la cárcel para media vida

va a reconocer la república de cataluña va a actuar como un pueblo

porque reconocer la república independiente de cataluña es estar con los jordis y con

y no con los tricornios kataluniako errepublika aitortzea

aukeratu beharra esto no es cuestión de si lo queremos despacito pasito a pasito o a toda caña no

de responsabilidad de honestidad de valentía también es tiempo de decidir qué camino queremos seguir y con quién lo queremos recorrer

por mejor decirlo tres agendas una mediática otra judicial y otra política sobre la mediática que es muy importante y muy influyente incluye a las redes sociales no me voy a pronunciar porque no me corresponde sobre la judicial

muy resumidamente que la prisión incondicional decretada ayer por la titular del juzgado central de instrucción número tres me parece desproporcionada absolutamente innecesaria y encima contraproducente creo además desde un punto de vista más jurídico que es inconsistente tanto desde el punto de vista del encuadramiento de los hechos en el marco del delito de rebelión e invito a sus señorías a que se lean

parlamentarios del vigente código penal en esa materia y las aportaciones que el grupo parlamentario vasco en el congreso y en el senado hicieron de manera que quedara patente que solamente era rebelión el levantamiento público y violento

pero me parece también inconsistente desde el punto de vista de la valoración de las circunstancias que concurren para decretar la prisión provisional

considerar que hay peligro o alto peligro de destrucción de pruebas por parte de consejeros que están destituidos y no pueden acceder a sus despachos parece absolutamente sarcástico

onartu duena hitzez hitz hartuta zera da declarar el inicio de la apertura del proceso constituyente berriro irakurriko dizut declarar el inicio de la apertura del proceso constituyente

señor rajoy esaten zuen bere idazkari nagusiak duela egun batzuk nos veremos en las urnas are gehiago

no le da miedo las urnas eta inork zalantzarik bazuen

argitu zuen joan den asteartean bruselan egindako adierazpen hartan tomamos las elecciones como un reto democrático los retos democráticos

en el terreno de la democracia en el que somos más fuertes y en el que siempre hemos ganado eta hori guztia gutxi balitz asamblea nacional de cataluñako buruzagiek

qué pena estamos con vosotros y qué le vamos a hacer y qué mal reconocer

es comprometerse con cataluña es ayudarles

a quien le ataca también eso es lo que necesita cataluña a parte del respeto efectivamente eta begira gauza askotan gu ez gara

el día veintisiete de octubre de dos mil diecisiete a la votación y aprobación en el pleno del parlament de la declaración unilateral de independencia

lehendakariak esaten zuen baita ere subrayar la prioridad de evitar cualquier tipo de fractura social o política y ser

mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburuak erkoreka jauna qué medidas se van a adoptar desde el gobierno vasco para garantizar la accesibilidad universal
en aquellos espacios públicos dependientes del gobierno como escuelas y centros de salud besterik ez mila esker eskerrik asko

gracias señora presidenta señora guanche la semana pasada estuve en representación del gobierno vasco en la jornada que organizó eginaren eginez con motivo de la celebración de los veinte años de la ley

y otras personas así como de exponer la política que ha seguido y va a seguir el departamento en esta materia el cuatro de diciembre se cumple dos décadas de esta ley que iba más allá de la eliminación de obstáculos y barreras arquitectónicas para quienes sufren limitaciones físicas

igualdad de todas las personas dos décadas después la aspiración de esta ley ciertamente avanzada sigue vigente se han dado importantes pasos para la incorporación de la exigencia accesibilidad

los espacios públicos los edificios y los sistemas de transporte y de comunicaciones

sí pero tenemos que mirar lo que todavía nos queda por hacer que todavía es mucho incluso en algunos edificios públicos

del ararteko precisamente para recordar lo que todavía falta se creó en su momento el consejo vasco para la promoción de la accesibilidad

el gobierno vasco el resto de administraciones vascas las asociaciones que representan a las personas con alguna discapacidad funcional

y los colegios profesionales es un consejo vivo

este próximo lunes con la voluntad de darle nuevo impulso para que lidere la implantación del concepto

en todos los ámbitos de nuestra sociedad esto implica un cambio de mentalidad muy sustancial por la ley del noventa y siete

que requería eliminar barreras a un concepto de accesibilidad e inclusión para todos ahora

de accesibilidad universal como aspiración a la igualdad social

incluidos los entornos digitales por eso tras escuchar a este consejo nuestro departamento

al lehendakari activar una estrategia vasca para la accesibilidad universal entendida como un camino para avanzar en la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida

concebimos esta estrategia como una apuesta integral de país como lo fue la ley que involucre a todas las instituciones así como las entidades y asociaciones concernidas

para todas las áreas de gobierno tendremos que abordar la identificación y la resolución de las carencias que todavía subsisten

y los avisos que nos hacen desde las asociaciones y personas afectadas

jauna mila esker erantzunagatik el pasado dieciocho de febrero de dos mil diecisiete por iniciativa

grupos presentes en esta cámara se llegó a un acuerdo que obligaba a realizar una evaluación sobre las necesidades existentes además está el informe del ararteko además está lo recogido en las jornadas hoy

este acuerdo nos consta que se está avanzando en un plan de lectura fácil cuestión que desde luego aplaudimos pero consideramos que no es suficiente porque la accesibilidad tiene que ir más allá de la mera accesibilidad de informática digamos y desde luego consideramos que hay problemas graves que usted ha reconocido y con lo que entiendo que no tocan porque ya

ponerle una solución pero nos preocupa dónde está la puesta estratégica por la accesibilidad una ley que lleva veinte años aprobada y veinte años incumplida

pero no me ha dicho cuándo ni me ha dicho dónde está la dotación presupuestaria para que esa estrategia que ustedes quieren poner en marcha vaya adelante yo le agradecería que lo dijese cierto que en su departamento hay un monto económico más bien pequeño

a accesibilidad y me gustaría saber ya que me ha trasladado cuál es el plan del gobierno dónde se va a sustentar económicamente el desarrollo de este plan a nosotras nos preocupa porque entendemos que hay cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana pero nos preocupa que el poco a poco o

solo afecte siempre a las mismas personas nos preocupa que siempre las más vulnerables sean las que tienen que esperar o sea las que ven mermados sus derechos por otro lado y también me gustaría

el ararteko el otro día nos recordaba que la accesibilidad tiene tres patas la movilidad la comunicación y la información entiendo que esta estrategia debería abordar esas tres patas entiendo que también esto lo van a hablar con el consejo

nos pondrán la información lo antes que dispongan de ella pero nos gustaría saber también

recogemos con alegría el compromiso con esta estrategia y esperamos que se desarrolle pronto seguiremos desde luego vigilantes al cumplimiento de la ley

inciden directamente en lo que es la accesibilidad varias partidas una es la que se refiere al programa renove rehabilitación de edificios y viviendas que

una cuantía de cinco coma cinco millónes de euros además tenemos otra partida

de actuaciones de accesibilidad en los municipios de tres coma tres millónes tenemos una partida genérica de regeneración urbana rehabilitación de edificios en el que una parte importante se destina al tema de accesibilidad en los edificios de vivienda ascensor y rampas etcétera con lo cual estamos actuando

no solamente son los edificios públicos los edificios de las comunidades

zuzentzen diogu sailburuari el decreto trece barra dos mil seis de dos de febrero de intervención integral en atención temprana a la comunidad autónoma del país vasco trata de establecer un marco

temprana con el objeto de fijar las normas básicas para organizar coordinar el conjunto de intervenciones que tienen que acompañar a la atención temprana en los distintos ámbitos como son el ámbito de la educación sanidad y servicios sociales

en donde se coordinen las distintas actuaciones de estos tres ámbitos a los que acabo de hacer referencia a nadie se le escapa que el desarrollo infantil se caracteriza en los primeros años por la adquisición de funciones tan relevantes como son el control postural la autonomía en el desplazamiento

verbal la interacción social y del desarrollo infantil podemos decir que es un proceso absolutamente dinámico complejo que se

y sobre una base genética en la que interactúan además diversos factores biológicos psicosociales y cualquier actuación

que puede llevar a trastornos en el desarrollo de los niños y niñas o en riesgo de padecer algún trastorno o alguna alteración en el desarrollo como es obvio estas alteraciones se pueden producir en cualquier

infantil y según además la propia exposición del citado decreto se hace referencia a que se puede ver afectado incluso un diez por ciento de la población infantil por lo tanto estamos hablando de un problema

magnitud y relevancia que requiere de la atención necesaria por parte de los poderes públicos como decía la atención temprana es un conjunto

programas y actuaciones concretas dirigidas a la población infantil entre cero y seis años

de prevenir o dar respuesta si ya estamos ante un trastorno en el desarrollo

se trata de actuaciones que pueden ser transitorias o

que ya tienen esos trastornos que presentan trastornos y que tienen el riesgo de padecer esos trastornos

que en el año dos mil ocho se produjo un proceso de reflexión en relación a esta y sobre todo con la necesidad de establecer un modelo coordinado de atención tanto entre las diputaciones y entre el gobierno vasco porque

era bastante diferente y por lo tanto había una necesidad de coordinar y de establecer un marco común de actuación y sobre todo que deslindara claramente

al gobierno vasco en el ámbito de la educación servicios sociales y sanidad esta reflexión se produjo en el consejo

a raíz de esta reflexión en el consejo se elaboró un documento del modelo de atención temprana que debía

también un modelo multidisciplinar un modelo de atención integral

se aprueba el citado decreto del dos mil dieciséis y tenemos que decir desde el grupo popular que nosotros y además en

de elaboración del citado decreto intervinieron también las tres diputaciones y como sabe la señora consejera en ese momento tanto la diputación de gipuzkoa como la diputación de álava y diputación de bizkaia

en concreto la diputación de gipuzkoa y la diputación de álava señalaron

a que el citado decreto o el citado borrador en ese momento

en las competencias del gobierno vasco tenemos que decir que desafortunadamente esas sospechas que nosotros ya manifestamos

se han cumplido y que el citado decreto del dos mil dieciséis no ha dado los frutos esperados y que presenta claras disfunciones que creemos que este gobierno tiene

que arreglar que tiene que paliar o subsanar y las sospechas llegaron en el sentido de que al no estar claramente deslindadas

tiene atribuciones específicas al gobierno vasco como es sanidad educación y servicios sociales pues esas

supuesto una carga adicional en las diputaciones forales hemos

denunciado también en las juntas generales de los tres territorios y también en concreto

en relación a esta cuestión también en las juntas generales llevados de la mano del partido popular

a los servicios incorporación más tardía a los tratamientos merma de las intensidades de los tratamientos una vez prescrita

realizada la valoración y prescrito el tratamiento correspondiente por el equipo de valoración de atención temprana

y todo esto ha venido como consecuencia de que el gobierno vasco no ha asumido sus responsabilidades

y concretamente también porque en el citado decreto no aparecen establecidas claramente las responsabilidades que corresponden al gobierno vasco

que refleja claramente las disfunciones de toda esta situación que es que de los tratamientos realmente que se han prescrito por parte del equipo de evaluación de atención temprana cuántos finalmente ha asumido el gobierno vasco y cuántos ha asumido

las diputaciones todo esto que nosotros ya

no estaba haciéndose bien ha venido como consecuencia de un decreto redactado de forma muy generalista en donde se dejaban claramente

pudiera eludir las responsabilidades que tenía que asumir en virtud de sus competencias y la falta de concreción a la que me he referido en las competencias en los ámbitos concretos de sanidad educación y servicios sociales todo ello

y sobre todo teniendo en cuenta que la atención en este periodo y por la importancia de una atención rápida cuando puede haber

ágil y en el menor tiempo posible de cara a estimular

que es necesaria para en la medida de lo posible recuperar el desarrollo normal de los niños y niñas yo le pregunto señora consejera si a ustedes

de la puesta en marcha de este decreto que como digo inicialmente cuando las tres

gobernadas por el partido nacionalista vasco y el partido socialista después de las últimas elecciones ustedes se plantean algún tipo de autocrítica si se plantean realizar alguna modificación del citado decreto y por eso le hemos formulado esta interpelación con la pregunta concreta de que

van a asumir las competencias y las obligaciones que le corresponden tanto en virtud de la ley de servicios sociales como el decreto de cartera y si se plantean

de las deficiencias que se han demostrado en la aplicación de este decreto modificar la normativa de cara a clarificar definitivamente las competencias que corresponden al gobierno vasco y a los tres ámbitos concretos sanidad educación y servicios sociales que a día de hoy

resquicios que además está llevando a que el gobierno vasco no asuma las responsabilidades y competencias que tendría que asumir y eso suponga una carga añadida a las diputaciones forales besterik gabe

presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi el consejo vasco sociosanitario junto a una serie de iniciativas de las tres diputaciones forales buscaba la definición de un modelo coordinado como usted decía de atención temprana y promovió en el año dos mil diez una reflexión conjunta

ese texto sirvió de referencia para que una comisión técnica interinstitucional

origen del decreto trece barra dos mil dieciséis de dos de febrero de intervención integral en atención temprana en la comunidad autónoma del país vasco el objeto de dicho decreto es regular la intervención integral prestada en el marco de la responsabilidad pública

y no establecer las actuaciones cuyo desarrollo corresponde a los sistemas por tanto nos corresponde determinar pero no establecer cuáles son las actuaciones como dice el propio decreto el desarrollo infantil es un proceso dinámico muy complejo en el que

interactúan múltiples factores biológicos y psicosociales la atención temprana está dirigida a la población infantil de cero a seis años con trastornos en

en esta intervención participan los sistemas de salud educación y los servicios sociales que desarrollan actuaciones en el marco de sus competencias y de los diferentes profesionales de orientación interdisciplinar la normativa desarrollada para la atención temprana

de las personas profesionales de dichos sistemas el marco teórico práctico multidisciplinar y el concepto de atención temprana

entre estos tres sistemas el modelo integral e interdisciplinar propone otorgar la responsabilidad principal en los mecanismos de coordinación interinstitucionales al sistema vasco de servicios sociales por razones de funcionalidad

como derecho subjetivo a partir del día veintiséis de septiembre del dos mil dieciséis

conviene recordar que la ley de servicios sociales en su artículo treinta y uno indica que el gobierno vasco en el ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales coordinará

a través de la elaboración de la normativa necesaria para la articulación del propio sistema de servicios sociales en base a los principios rectores recogidos en la ley

en el decreto de atención temprana en su artículo cinco se establecen y definen los ámbitos y los niveles de la intervención por tanto se establecen tres ámbitos el sanitario

y asistencial a través de los siguientes niveles de intervención el primero a nivel primario incluyendo todas aquellas actuaciones en los tres sistemas tendentes a evitar las condiciones que puedan llevar a la aparición de deficiencias o trastornos en el desarrollo infantil en el segundo nivel el nivel secundario incluyendo todas aquellas actuaciones dirigidas a detectar y diagnosticar precozmente la aparición de deficiencias o trastornos en el desarrollo o el riesgo de padecerlos con el fin de evitar o reducir

se desarrollan básicamente a través de la aplicación de tratamientos sanitarios

en el diseño y aplicación de adaptaciones curriculares así como de planes de trabajo personalizados que garanticen el desarrollo de las competencias básicas la prescripción de productos de apoyo y adaptaciones del medio físico y en el diseño y aplicación de programas de intervención social y en el nivel terciario

trastornos o disfunciones observadas en el desarrollo del niño o niña se desarrollan a través de todas las intervenciones dirigidas al niño o a la niña

y es una intervención habilitadora rehabilitadora terapéutica y de respuesta a las necesidades familiares y del entorno además en dicho decreto se articula también en su artículo octavo la estructura de coordinación interinstitucional

interdisciplinar e integral de la intervención de atención temprana esta coordinación tiene la finalidad de garantizar una colaboración y coordinación efectivas entre los sistemas de salud educativo y de servicios sociales

competente en esta materia de servicios sociales como es el consejo interinstitucional de atención temprana

en relación con la financiación de los equipos de intervención de atención temprana se están elaborando en estos momentos los pertinentes estudios de gasto incurrido en la atención de estos niños por parte de los tres sistemas

el educativo y el sanitario y es la comisión técnica interinstitucional de atención temprana la que está llevando a cabo este estudio que elevará cuando esté concluido al consejo interinstitucional de atención temprana para que determine lo que consideremos oportuno

de salud y de empleo y políticas sociales y estas prestaciones se desarrollan de acuerdo con las respectivas carteras de prestaciones y servicios así también como atendiendo

para cada uno de los niños así pues la sanidad vasca

tanto en lo que afecta en la parte preventiva como la terapéutica en los mismos se citan por ejemplo el programa de salud y mujeres el programa de

la articulación de la pediatría de atención primaria la articulación de los servicios de psiquiatría infantil o el programa de detección precoz de la sordera infantil mención especial también merece el programa de atención integral de niños con necesidades

liderado por salud en coordinación con los servicios sociales y el departamento de educación que se está afianzando en este momento en el territorio de bizkaia y que se va a extender al resto de los territorios las prestaciones que el sistema sanitario de euskadi ofrece a todas las personas están recogidos en el real decreto mil treinta barra dos mil seis

por el que se establece la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud así como en normativa posterior de desarrollo sobre la que el propio sistema vasco ha desarrollado servicios o prestaciones por encima de dicha cartera de servicios comunes como por ejemplo el cribado neonatal de las enfermedades congénitas

complementarios con su solo presupuesto la prestación de todos los servicios para atender las necesidades específicamente sanitarias de las niñas y niños comprendidos entre los cero y seis años

todos los servicios educativos responden al objetivo de garantizar el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y alumnas con necesidades especiales de apoyo educativo

se incluyen todos los que puedan necesitar una intervención temprana y sostenida en el tiempo destaca la creación de los servicios de apoyo a la educación berritzeguneak

y de manera más específica las de necesidades educativas especiales por su parte el plan estratégico de atención a la diversidad en el marco de la escuela inclusiva recoge entre sus metas el desarrollo del modelo interdepartamental de atención temprana en el ámbito de sus competencias en el ámbito de los servicios sociales se desarrollan dos grandes grupos de actuaciones por un lado las actuaciones en el ámbito de la protección

en el marco normativo de la ley de atención y protección a la infancia y adolescencia y por otro lado las actuaciones de promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y a la dependencia en el marco normativo de la dependencia y la normativa autonómica vigente en el ámbito de los servicios sociales

de servicios sociales por tanto en lo que respecta al gobierno vasco se asumen las competencias y no vemos necesaria la modificación de la normativa que usted menciona es más no se entiende que ahora se plantee una modificación de este decreto que tuvo tan alto grado de participación

lo que tenemos que seguir es mejorando en la coordinación para garantizar un servicio de calidad para los niños de cero a seis años en el ámbito de la atención temprana mila esker

bueno una alta participación podemos coincidir que tuvo todo el proceso de reflexión y de elaboración del borrador y definitivamente del decreto pero no consenso señora consejera porque usted sabe muy bien

cuando el debate y el proceso de reflexión ya se abre

usted ha hecho referencia también al año dos mil diez es decir mucho proceso de reflexión muchas opiniones y usted sabe precisamente que el grado de consenso antes de las elecciones municipales y forales del dos mil quince no había un grado de consenso por parte de las tres diputaciones en relación a este decreto y es más se aprovecha

que eran las que se oponían a la redacción del decreto y la regulación del decreto tal y como iba

señalado a raíz de ver las sospechas de que no se establecían claramente las competencias que corresponderían a cada una de las tres instituciones que el decreto era bastante generalista que dejaba resquicios todas esas sospechas sean confirmado por lo tanto puede haber mucha participación pero consenso total no

cuando el pnv tiene todas las instituciones y entonces da el visto bueno

a la aprobación de este decreto pero previamente usted sabe en ese momento

de vitoria pero que los borradores de este decreto no tenían el consenso de las tres diputaciones forales y a raíz

el decreto el decreto claramente deja resquicios por los que el gobierno vasco se escapa en la asunción de las competencias que tiene atribuidas y

sectores o ámbitos ha llevado claramente a una merma en la atención

era coordinar las actuaciones dar una atención integral y multidisciplinar y establecer un marco normativo común y también

fijación clara de las responsabilidades y las obligaciones de cada institución pues el citado decreto a tenor de los resultados pues no ha servido para mucho y por eso nosotros le planteamos si ustedes se plantean una reflexión modificar el citado decreto ahí están los datos los datos que se han preguntado

las juntas generales de álava que evidencian claramente que el funcionamiento del servicio de atención temprana tiene claras deficiencias por la propia regulación

del decreto que no delimita claramente las competencias de las instituciones y de los ámbitos educativo social y sanitaria y específicamente también pues la competencias

y eso lleva a que la función de las competencias del gobierno vasco que no asume las tenga que

las diputaciones y a nosotros lo que nos preocupa es que aparte de que no tenemos una aprobación del decreto

y así lo manifestamos en los citados órganos la posición de la diputación foral de álava que también coincidió en ese momento con la diputación de gipuzkoa gobernada

en la atención que se presta a en la atención temprana a los niños de cero a seis años estamos hablando de claro retrasos en las valoraciones

de tiempo más tarde en los que se incorporan los niños a los tratamientos de merma en los propios tratamientos de mayores listas de espera

han reducido considerablemente y todo eso ha llevado a que las diputaciones tengan que asumir

ha sido incapaz de delimitar claramente sus responsabilidades en este decreto por eso señora consejera creo que la pregunta es obvia y la respuesta también tenía que ser obvia las disfunciones están ahí las deficiencias están ahí

porque ustedes tienen que clarificar las competencias lo que no puede ser es que el gobierno vasco por una falta de clarificación de las competencias que le correspondan eso recaiga en otras instituciones que tienen que asumir el trabajo y las obligaciones

mahaiburu andrea bueno señora garrido las tres diputaciones forales aprobaron el decreto tuvo

consenso unánime por las instituciones competentes en la materia a la hora de la prestación del servicio de atención temprana y entendieron

que aprobaron el mismo que era un gran avance para mejorar la asistencia que a los niños de cero a seis años se estaba dando porque además el momento en el que se aprueba el decreto lo que se produjo fue una ampliación de la edad de atención de los niños porque hasta el momento se estaba atendiendo a los niños de cero a tres años por lo tanto las competencias ya estaban definidas

protagonistas que tenían que hacerse cargo de las necesidades que esos niños ya estaban también clarificadas y lo que se produjo fue un incremento de la edad de la atención

pueden tener gran importancia y si la atención a los menores se realiza a una edad temprana son evitables y también pueden ser total o parcialmente corregibles las consecuencias negativas de la mayoría de estas alteraciones pueden paliarse con un abordaje adecuado

incluso estas situaciones de mayor aceptación con un acompañamiento profesionalizado y especializado como el que se viene prestando por parte de las diputaciones previene tanto por parte de las tres diputaciones en el ámbito de los servicios sociales en el educativo

en el ámbito de la salud están favoreciendo que se disminuyan los desajustes asociados una mejora del bienestar infantil y también aumenta

y el gobierno vasco sí que está asumiendo sus competencias en materia de atención temprana

la cartera de servicios que a nivel estatal se han definido

superiores que mejoran esa detención precoz de los niños además también desde el departamento de empleo y políticas sociales hemos desarrollado y aprobado

por el que se aprueba la actualización y el instrumento para la valoración de la gravedad y las situaciones de riesgo y desamparo de los servicios sociales municipales

modelo balora no siendo un elemento directamente relacionado con la atención temprana sí consideramos que de manera tan esencial puede servir de apoyo a los servicios sociales en la prestación de dichos servicios y además

a los equipos de atención temprana a los evat es a quien corresponde la elaboración de los planes de atención

qué es lo que tiene que aportar cada uno de los sistemas y cuál es la forma de interactuar con ese niño para mejorar las condiciones en las que se encuentra ese plan recoge ese compromiso de actuación interdepartamental con las actuaciones previstas en cada uno de los ámbitos y para ello ya contamos con la participación también de los padres y de las madres en ese plan de trabajo

ya el pasado veintisiete de octubre se reunió el consejo interinstitucional de atención temprana en el que se aprobó por unanimidad el catálogo de títulos estudios y competencias profesionales que sirven para la acreditación de la cualificación profesional en materia de atención temprana evidentemente estamos trabajando

sistemas que tienen que trabajar para determinar cuál es la participación de cada uno de los departamentos tanto del gobierno como de las instituciones implicadas

se están dando avances en el mismo a través de los órganos de coordinación definidos en el decreto creo que es un marco bueno y que por el momento no tenemos previsto su modificación mila esker

gracias señora presidenta señores consejeros señorías buenos días a todos señora artolazabal registramos esta pregunta al conocer el dato de que cuatro mil familias vascas se enfrentaban en el último trimestre según la epa

un drama no lo voy a calificar de otra manera porque sé que a usted le preocupa tanto como a cualquiera de los que estamos aquí

el peso de la responsabilidad que tiene como consejera de empleo hoy nos hemos enterado

han encontrado trabajo en nuestra comunidad autónoma lo cierto es que

desde que usted ocupa esta responsabilidad y si cogemos los números de este año efectivamente el paro está descendiendo y parece ser que se va a cumplir el objetivo que marcó

situar la tasa de desempleo por debajo del diez por ciento cuando termine su gobierno pero

nos dicen que la creación de empleo estable un empleo bien remunerado en esta comunidad pues no van bien no van al ritmo de otras zonas de españa y eso nos preocupa porque podemos conseguir el objetivo de situar el desempleo por debajo del diez por ciento pero eso prácticamente se va a conseguir solo

en tres años o tres años y pico llegaríamos a situarnos por debajo de ese diez por ciento precisamente porque sé que esta situación le preocupa y porque hoy estará contenta porque el dato con el que nos hemos levantado es un dato muy positivo

qué políticas concretas urgentes están poniendo en marcha están llevando a cabo para la creación de nuevos puestos de

señor ruiz de arbulo usted hace mención a un dato publicado por la epa existen diferentes formas de medir el desempleo ya sabe usted la epa el índice de desempleo que tenemos en lanbide la epa

personas con lo cual no es la encuesta con la muestra más amplia

ya lo reconocimos yo lo reconocí personalmente que el último trimestre comparado con el segundo tenía unos datos negativos y que por tanto en lo que teníamos que fijarnos era la tendencia y creo sinceramente que la tendencia es una tendencia positiva

del mes de octubre son unos datos buenos más de mil novecientos noventa personas

y comparado con el mes de septiembre que también fueron datos buenos de desempleo entendemos que la tendencia es positiva y es a lo que nos tenemos que

en lo que son las recuperaciones y también con sus pequeños sobresaltos pero tampoco

bajar la guardia aunque la tendencia sea positiva los datos de contratación están mejorando los datos de afiliación a la seguridad social están mejorando

de las cuestiones que puedan surgir en la prensa o de estudios que se estén haciendo con los datos objetivos que tenemos en lanbide están mejorando hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar y este gobierno está

inversiones en el ámbito del empleo para fomentar el empleo y priorizamos lo que son actuaciones que favorecen la contratación de estos colectivos planes locales de empleo con más de diez millónes

diversos programas de contratación para jóvenes que también es una de las cuestiones el desempleo en la parte de los jóvenes está funcionando de una forma adecuada

porque tenemos que dar oportunidades a todos los colectivos y a todas las personas independientemente de su condición por tanto creo que todo lo que se destine a los programas de formación va tener como objetivo principal

esto se refleja en los datos y en las tasas de desempleo en euskadi la tasa actual de hoy es de un doce coma tres por ciento dos décimas menos que la del mes de septiembre y creo sinceramente que tenemos muchas cosas por hacer pero que la tendencia es positiva y tendremos entre todos que intentar afinar las políticas de empleo para que consigamos lograr ese objetivo tanto en cantidad como en calidad

sí señora consejera efectivamente entre todos usted lo ha dicho y nosotros le tendemos la mano

y de hecho lo hemos hecho usted se ha centrado mucho en el tema del desempleo y yo quiero centrarme en la creación de nuevos empleos los datos no son

hay dos formas de crear nuevos empleos el autoempleo y estamos a la cola de todas las comunidades autónomas en la tasa de emprendimiento luego no es una buena vía o no parece ser la que más funcione en esta comunidad o

para que existan nuevos contratos de trabajo hacen falta dos partes los empleadores y los empleados señora artolazabal ayer los empleadores nos decían que con la reforma fiscal que ustedes han planteado se van a destruir puestos de trabajo

si ustedes quieren que entre todos podamos poner en marcha políticas que funcionen para la creación de empleo

y podremos conseguir la creación de nuevos puestos de trabajo bien remunerados y estables muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna artolazabal andrea zurea da hitza

como ustedes y como toda esta cámara sí que deseamos que crezca

políticas encima de la mesa tanto en el ámbito de la formación como en el ámbito de la orientación para mejorar esa accesibilidad la política fiscal que se ha pactado entendemos que es una política que va a intentar por lo menos ayudar a las empresas y no generar problemas que impidan

si pusiéramos encima de la mesa políticas que vienen a destruir empleo y desde luego yo considero que nosotros somos un gobierno serio

alcanzado ese acuerdo también lo son y que espero los resultados sean positivos para generar empleo yo sinceramente me quedo con que la tendencia positiva en euskadi

gracias señora presidenta buenos días a todos buenos días señora consejera la verdad es que hay temas que parece

es extrema y que esa dificultad impide la resolución de los mismos y probablemente

que la creación de un registro de centros especiales de empleo sea uno de estos temas y es que la creación de este registro además no es baladí porque además de poder

a esos centros especiales de empleo también para poder acceder a las propias ayudas que el consejo de administración de lanbide por ejemplo

en ese registro pero además como decía para poder operar para poder presentarse a concursos es necesario estar inscrito en el registro en la legislatura pasada varias veces sobre la creación del registro de centros especiales de empleo en esta legislatura también hay pendiente

contestó que el registro de centros especiales de empleo debe estar necesariamente vinculado

en el que están ustedes trabajando y que suponga un desarrollo normativo por eso yo le pregunto señora consejera para cuándo va a llegar ese marco legal y para cuándo
va a ser posible la existencia de ese registro de centros especiales de empleo eskerrik asko

como bien dice señora llanos no es la primera vez que abordamos la cuestión de los centros especiales de empleo en esta cámara y más concretamente desde el día que se produce

esta es una cuestión en la que estamos trabajando estrechamente de la mano de entidades que representan a la totalidad de los centros especiales de empleo de euskadi como son ehlabe y berezilan

es evidente tanto en lo relativo al mantenimiento de los puestos de trabajo existentes como el impulso de la generación de oportunidades de empleo para estas personas y esa colaboración es indiscutible y ahí se constata en las líneas de trabajo

el registro de los centros especiales de empleo debe estar necesariamente vinculado a la elaboración de un marco legal como le contestaba en la pregunta por escrito que suponga un desarrollo normativo que recoja y estructure el conjunto de las políticas específicas de apoyo al empleo de las personas con discapacidad no solamente lo que es el registro sino todas las políticas relacionadas con el ámbito del empleo y de la discapacidad

ser el paraguas que articule el registro de los centros de empleo y también para desarrollar dichas políticas activas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad consideramos que este marco es más amplio que supondrá mejorar que no nos debemos quedar únicamente con el decreto para regular el registro

y en base a estos principios y criterios esperamos tener a principios del dieciocho un borrador de decreto consensuado y con el apoyo de los colectivos con los que estamos trabajando para poder dar inicio a la tramitación

parece que vivimos en el día de la marmota pero es que es verdad en este tema concretamente

una fecha a ver si es posible pero la misma respuesta la dio el señor toña cuando fue interpelado por el señor itxaso en la anterior legislatura pero es que

a la representante de eh bildu cuando le preguntó por escrito y a lo mejor cinco meses es verdad que no son muchos

activas que usted dice que son necesarias pero es que desde el dos mil diez tienen ustedes la competencia y existe un borrador de decreto desde el año dos mil catorce

a principios del dieciocho oiga cuatro años cuatro años para ser somos ustedes se jactan en muchas ocasiones que somos los campeones de la eficacia

tiempo yo les decía ayer una cosa es reclamar la competencia y otra cosa es ejercer bien esa competencia

y no lo han hecho y para hacer el registro tienen un borrador de registro de centros especiales de empleo desde el año dos mil catorce estamos a finales del dos mil diecisiete y ahora nos dicen que para principios del dos mil dieciocho puede que ese registro vea la luz yo me alegro de que

desarrollo de las políticas activas para fomentar el empleo de las personas con discapacidad me alegro que ese registro vea la luz a ver si es verdad a principio de dos mil dieciocho pero se lo digo en muchas ocasiones más importante que reclamar la competencia es saber ejercer

que tener la competencia es tener gestores competentes y está claro que con relación a este asunto ustedes ni ejercen bien la competencia ni son gestores competentes porque mientras otras comunidades autónomas hace tiempo que tienen desarrolladas esas políticas y hace tiempo que tienen el registro

hoy en día existen en euskadi centros especiales de empleo que no pueden acceder a concursos que no pueden acceder a ayudas públicas porque ese registro no existe y eso es su responsabilidad
esperemos que para principios del dos mil dieciocho sí puedan hacerlo muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

yo señora llanos soy consejera desde hace diez meses creo más o menos sé y me consta que este tema ha sido debatido arduamente en este parlamento y me consta a mí también que ha habido muchas dificultades para poder llegar a tenerlo en el plazo que bueno pues que mis compañeros

no pudimos lograrlo creo que somos gestores competentes creo que las competencias las ejercemos de una forma adecuada y si no vayamos a ver los resultados

nosotros tenemos un buen posicionamiento en el ámbito del empleo para las personas con discapacidad a pesar de ser la última comunidad del estado que recibió la transferencia de las políticas activas creo que si ustedes ven las tasas de desempleo de euskadi de personas con discapacidad

tan malos no seremos y tan mal no haremos las cosas pero dicho todo esto creo que

es lo que a mí me han encomendado y en lo que estamos trabajando de una forma importante e intensa y lo estamos haciendo además señora llanos con las entidades que trabajan

en materia de empleo para personas con discapacidad porque nuestro objetivo

el generar un decreto que sirva para registrar las empresas o los centros especiales de empleo creo que a través de estas iniciativas vamos a regular un decreto

para incentivar la contratación de las personas con discapacidad de verdad señora llanos a veces cuesta yo me gustaría hacer las cosas de una forma más rápida pero bueno yo prefiero hacer las cosas un poco más tarde y a hacerlas bien que no rápidas y mal es verdad que llevamos mucho tiempo pero es verdad que yo

diez meses le he anunciado que para primeros del año dieciocho espero tener ese borrador con el mayor consenso y si puede ser unánime

con discapacidad eskerrik asko sailburu

en las obras del centro comercial mercadona de donosti la empresa constructora sin ningún tipo de permiso

de tierras contaminadas y las deposita en un paraje natural

municipal de san sebastián cerca del parque rural unanue

esta es la foto del espacio donde se vierte los veintitrés mil metros de tierras contaminadas el equivalente a cinco campos de futbol con una altura de cinco metros este vertido se hace además en un espacio de interés

que al principio es así y después queda así como digo la empresa constructora incumple todas las normas en materia

y mi pregunta es qué va a hacer usted que va a hacer su departamento para restaurar la legalidad

para sancionar a los responsables de todo esto y para conseguir que este espacio natural vuelva a estar como estaba antes de esta ilegalidad

señor becerra como usted seguramente conoce la competencia para autorizar rellenos de tierras y rocas de un determinado volumen y procedencia corresponde al municipio afectado y en algunos casos

y la dirección de patrimonio natural de medio ambiente dentro de este procedimiento el nueve de marzo del dieciséis

condicionado al cumplimiento de varias medidas dirigidas a acotar la afección al entrono natural la fauna y los cursos de agua posteriormente el veintisiete de mayo la empresa que realizaba las obras de urbanización de la zona comunicó la detección de un punto sospechoso de contaminación donde estuvo la cantera belartza y además de una

que había indicios de estar potencialmente contaminada y pidió autorización para retirada de esos materiales

y se autorizó la excavación prevista en paralelo la

de mayo a consecuencia de un escrito de una organización ecologista que denunciaba actuaciones presuntamente irregulares en el relleno y respondió asimismo a un escrito del ararteko

de ese año también ura a instancias de esta misma organización instó a la empresa a retirar un vado y una pista de acceso

finalmente el trece de octubre del dieciséis comprobaba la correcta gestión de los materiales cavados se dio por finalizado todo el expediente sin que se considerara necesario

otras medidas adicionales por supuesto nuestro departamento está prestando toda la colaboración al juzgado de instrucción número cuatro de donostia san sebastián

y así lo hizo el tres y el treinta de noviembre pasado con respuesta a la información sobre el asunto solicitado por el juzgado lo último que nos consta es un escrito de denuncia realizado por las

el pasado mes de julio tras analizar su contenido desde el departamento se ha dado traslado de denuncia al ayuntamiento de donostia san sebastián

y la dirección de trabajo comunicándoselo así a las asociaciones denunciantes
esto es lo que le puedo comentar a día de hoy de este asunto eskerrik asko arriola jauna

señor consejero para cuando ustedes fueron a las obras del centro comercial mercadona ya no encontraron las tierras porque se las habían llevado han perdido ustedes durante meses veintitrés mil metros cúbicos de tierras contaminadas

de lo que quedaba de lo que quedaba en el solar y le dijeron tres cosas a la constructora uno que esas tierras no eran limpias dos que esas tierras tenían que ir a un vertedero autorizado

esas tierras en las obras del mercadona bien pues no solamente

en ese otro paraje pero además siguieron utilizando las tierras en las obras del mercadona fíjese el color que le he enseñado antes estas mismas tierras están aquí aquí está el centro comercial las han seguido utilizando en el centro comercial sin hacerles caso a su requerimiento pero además las han esparcido por media gipuzkoa fíjese en astigarraga debajo de la autovía

material mercadona tal cual es que a día de hoy

no lo tienen ellos y no lo tiene el ayuntamiento de donostia san sebastián que ni siquiera paralizó las obras y que además

le dio la autorización de relleno en veinticuatro horas a la empresa constructora mi pregunta es a quién tiene usted miedo tiene usted miedo a la empresa constructora

o tiene usted miedo al ayuntamiento de san sebastián tiene usted miedo al señor gasco

yo le pregunto si usted fuera una de las familias de ese barrio y de repente le ponen en un espacio natural unas tierras por un tamaño equivalente a cinco campos de futbol y le destruyen todo el espacio natural cómo se sentiría

yo le voy a decir una cosa este asunto como bien ha dicho usted está en la fiscalía está en la fiscalía por delito ecológico

está siendo investigada la empresa constructora está siendo investigado el ayuntamiento de san sebastián y a día de hoy

no ha hecho lo que tenía que hacer asumirá usted las responsabilidades en caso de que la fiscalía determine que efectivamente aquí hay un delito ecológico eso le pregunto

señor becerra el emplazamiento que hace referencia no está inventariado como suelo potencialmente contaminado por lo que el departamento

existen indicios presentados por la empresa lógicamente no puede saberlo antes en las documentaciones de denuncia que se nos han presentado hay juicios de valor pero tampoco se acredita nada de los análisis que se hacen en el emplazamiento lo que se desprende es que las tierras de excavación

lo que nos consta es que en relación con estos suelos es que el material

vertido en vertederos de residuos inertes y residuos no peligrosos también se detectaron algunas

y desde luego cualquier situación que se hubiera podido detectar por parte del departamento como usted se puede imaginar hubiera sido atendida yo no le tengo miedo a nadie a nadie ni a ninguna empresa

usted sabe cómo funciona nuestro departamento porque lo conoce perfectamente

y a la normativa de gestión de residuos y protección de medio ambiente y de lo adecuado no se desprende las

baina zure iritziari buruz galdetuko dizugu gaurko honetan le hemos escuchado en repetidas ocasiones señor azpiazu

sistema fiscal ya que en sus propias palabras la presión tributaria no es mayor que en el resto del estado español y es menor que en europa por lo que se podría pensar que hay una vía para hacer algo sin embargo

ha dicho en todo momento que la reforma fiscal que usted pedía no iban a ser sino meros ajustes fiscales señor azpiazu

presentado sus normas relativas de las medidas fiscales

en el pleno de control le dije que el gobierno vasco había aportado una serie de medidas enfocadas a evitar la elusión y evasión fiscal alineándonos con el resto de los sistemas

tras la negociación entre los partidos políticos las medidas anti elusión que finalmente se han acordado

europeo por ejemplo la revisión de los artículos relativos a la eliminación de la doble imposición nuevas modificaciones en el régimen de patent box y otras medidas como la limitación de la compensación

asimismo se limitan la aplicación de deducciones y la exención por reinversión únicamente a activos con finalidad vinculada a la actividad económica el impuesto de sociedades que se ha presentado pretende asegurar el equilibrio para incentivar la actividad económica y generar empleo de calidad y garantizar la recaudación

las políticas públicas de hecho busca adaptarse incluso antes del tiempo obligatorio dos mil veinticuatro a la nueva directiva de la unión europea relativa a la anti elusión como le he dicho además de incrementar la recaudación también es esencial incentivar

se han acordado medidas que adecuan la deducción por creación de empleo con vinculación a la calidad del empleo y al salario la revisión de los requisitos de la deducción por inversión en activos

o la inclusión de la regulación necesaria para la creación de los fondos que incentiven la innovación todas ellas han sido acordadas entre varias instituciones

y no me contesta le he preguntado si está usted contento o no azpiazu defiende una reforma fiscal estructural consensuada y con sosiego esto es literalmente lo que usted decía ante la asamblea de la confederación de empresarios de bizkaia

de fondo estructural ya que no se puede hacer cada dos por tres y diseñada con tranquilidad sosiego y el máximo consenso en palabras de usted mismo de verdad puede defender usted señor azpiazu

de verdad es este burdo maquillaje estos ajustes que tanto ha perseguido el señor rementeria lo que usted defendía como una reforma fiscal de fondo y estructural de verdad cree usted que esta reforma fiscal ha sido consensuada con algún grupo de la oposición

que es de recibo que la prensa sepa los detalles de la misma antes que los grupos que integran la oposición en algunos momentos señor azpiazu sabía más la prensa

decía usted señor azpiazu que apelaba a la responsabilidad colectiva de todos habrá que pasar la boina para tener suficiencia financiera

pasar la boina era sinónimo de una reforma fiscal en profundidad una reforma fiscal como la que el lunes pasado presentamos desde nuestro grupo parlamentario como dejamos claro entonces si se quiere se puede conseguir que nuestras instituciones tengan la posibilidad de recaudar más de garantizar mejores servicios públicos

la que de verdad mueve el empleo las pymes los autónomos y las cooperativas tengan más facilidades para su actividad

la ciudadanía la inmensa mayor parte de la gente vería más facilidades para llegar

reactivar el consumo o sencillamente para pagar lo que en justicia deberían pagar en impuestos

que pagan lo que a otros les permiten eludir al fin y al cabo señor azpiazu planteamos el lunes darle una situación a situaciones que llevan mucho tiempo enquistadas

por ello podemos naturalizar como no podemos naturalizar que sigan existiendo vacíos en nuestro sistema tributario

eludir sus obligaciones hablábamos hace dos semanas en este mismo parlamento sobre capitanes y marineros señor azpiazu yo sinceramente creía que era usted quien dirigía el barco cuando realizaba estas afirmaciones antes de verano

que nuestro grupo parlamentario estaba comprometido a dialogar para conseguir

pero lamentándolo mucho y sobre todo lamentándolo por la gran mayoría social que sigue con la soga fiscal al cuello he de decirle que le han robado el timón y que ese pasar la boina

y la nuestra le he dicho que se han alcanzado las medidas posibles y reales

bidegarritasuna eta errealismoa le gustan las metáforas marineras yo sinceramente le quiero decir que no es una cuestión de

de tener claro el rumbo siguiendo su metáfora

acabamos de presentar un proyecto de presupuestos en el que ocho de cada diez euros van a gasto social

y se apuesta por el desarrollo económico la buena marcha de la economía permitirá a las empresas aumentar los salarios

y personas hace un mes le dije que euskadi ha de seguir siendo un país serio reitero que necesitamos certidumbre y seguridad jurídica euskadik

behar du este gobierno tiene muy claras las necesidades económicas para cumplir nuestros compromisos con la ciudadanía

siempre desde la óptica de la viabilidad y del realismo eskerrik asko eskerrik asko

como décimos en las portadas de los periódicos nos hemos encontrado con un problema puntual en una escuela y digo puntual porque la mayoría de estos casos no salen a la luz pero el hartazgo de las familias hace que la situación se vuelva insostenible

parece que desde el gobierno ya han visto el problema y las medidas pasan por un plan por un plan estratégico de alimentación saludable un plan con objetivo a mil días y digo bien a mil días

esperemos que no tenga por objetivo acallar voces que ponen en duda un modelo más que cuestionado en la gestión de los comedores a priori el plan es necesario y bueno como prevención pero como tenemos duda de su eficacia hemos pedido ya la comparecencia de los tres departamentos en el que participan para que especifiquen qué medidas van a tomar

esta es la gran duda un punto prioritario de este plan son los comedores escolares cuyo título es puesta al día tricentesimo sexagesimo de comedores

euskal herria bildu estará a su disposición para trabajar acabo con la pregunta muy concreta qué garantía tiene el departamento de educación para que los menús en los comedores de los centros educativos
sean de calidad y saludables qué garantías les dan las empresas para cumplir lo establecido eskerrik asko eskerrik asko lopez de arroyabe andrea erantzuteko

eta adituek ontzat eman zituzten por parte de la empresa suministradora se verificó todo el procesado de la menestra

desde la recepción hasta el envasado la mercancía recibida la trazabilidad y la tipología

en otros centros fueron servidas cinco mil quinientos sesenta y uno raciones concluyendo que se trataba de una única incidencia

estuviera dentro de algún trozo de vegetal los proveedores de verdura envasada disponen de sistemas de control de calidad y de eliminación de elementos extraños durante el lavado troceado y procesado de verduras como consecuencia de este análisis el proveedor de materia prima fue informado del mismo y como medida correctora y preventiva intensificó los controles de supervisión en toda la producción

dice que su departamento está comprometido con la calidad no debo ponerlo en duda entiendo que debe ser así que ha habido un protocolo y una verificación entiendo que también debe ser así y que es una única incidencia bueno desde luego no ponemos en duda que los controles posteriores ha habido y bueno eso está claro

una cosa puntual sabemos que pasa desde eh bildu pedimos cosas muy concretas porque no solo vamos a hablar de lo que pasó en la escuela de muskiz tenemos encima de la mesa

pedimos desde eh bildu cosas muy concretas un control estricto de las empresas no solo en la calidad

sino en las condiciones tampoco solo en las condiciones laborales que ofrecen una

obligar digo bien obligar a elegir un modelo de gestión un modelo de gestión que ahora se llama directa

sino también de educar a las personas con responsabilidad en su salud y en su entorno jangeletako elikaduran ere erabakitzeko eskubidea eta horregatik gaur gure platera gure aukera da eskerrik asko

la calidad nutricional de todas las propuestas de menús son analizadas por personal debidamente cualificado siguiendo el enfoque ofrecido por la estrategia para la nutrición actividad física y prevención de la obesidad

este plan tiene una doble vertiente dentro del modelo de gestión de comedores escolares de gestión directa del departamento una mejora de la cualificación profesional

del análisis de peligros y puntos críticos de control que son sistemas de autocontrol sanitario de obligado cumplimiento en nuestros comedores escolares amaitzeko bi gauza aipatu behar dira

argitaratuta cambio en la programación de e te be dos para dar cobertura cataluña

gracias presidenta buenos días consejeras consejero señorías bien vamos a hablar de la carretera vamos a hablar

un tramo peligroso hay graves problemas se identifica por parte de los responsables de la junta de administrativa de seguridad vial en la nacional

que se ejecutan el pasado

registró un escrito ante el gobierno vasco en el que realizaba una serie de solicitudes relativas a las medidas de seguridad en la vía pública concretamente en la carretera de la red de interés preferente nmenos ciento cuatro y por qué

con mucho tráfico con casas al lado de la carretera cercana a un acceso transitado del parque de salburua

con las de uso del transporte público con parada de transporte público

de la tercera edad cerca o sea que con tráfico con aparcamientos con cruces por parte de los peatones de la carretera que a veces sobre todo en invierno tiene

o sea que hacía una serie de cuestiones de identificaciones de problema la junta administrativa de arkaute y una solicitud una serie de solicitudes que tenían que ver con la regulación semafórica con la instalación de un radar fijo ante el incumplimiento reiterado de la señalización vertical de la zona sí que se reconoce que

la competencia de la junta administrativa de señalar los tramos pues están ahí la señalización vertical pero lo que pasa es que se incumple se incumple de una manera reiterada

por parte de muchos conductores y teniendo en cuenta además que es una zona

con tráfico de peatones y con transporte público y parada como decía antes en ese sentido

formulada por la junta de arkaute en relación con las medidas de seguridad entendemos que es una cosa

que deberá dar una respuesta muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko beltran de heredia andrea zurea da hitza

que los vecinos y las vecinas de arkaute se preocupen por la seguridad y actúen

con señales pero es verdad no hay pasos de cebra o controles de semáforos porque es una nacional

administrativa traslade esta preocupación y trate de buscar soluciones pero como usted bien sabe y usted lo ha dicho aquí estamos hablando una zona periurbana que en estos últimos años ha tenido distintas

hasta el extremo por ejemplo de anularse el acceso a la

de estella disminuyendo de una forma considerable también el tráfico en esa zona actuaciones que han afectado también

y arkaute por eso como usted ha dicho el escrito que ha dado origen a esta pregunta es un escrito de dos mil quince un escrito que también ha dado origen a una moción

generales por tanto es un escrito que es anterior a las actuaciones que se han

y posterior a las medidas de señalización que se adoptaron en su momento por la diputación medidas que la diputación adoptó como titular de la

la junta administrativa de arkaute formuló a la propia diputación en noviembre de dos mil catorce lo que sí le puedo asegurar es que ni entonces ni

dejaremos nunca de analizar las propuestas que pudieran llegar desde la propia diputación o desde la junta administrativa pero propuestas que lógicamente se tendrán que poner sobre la mesa en esas

manifiesta interés por el tema pero claro la junta administrativa solicitaba de la dirección de tráfico del departamento de seguridad del gobierno vasco y dentro de las competencias que tiene atribuidas en materia de tráfico realice un estudio correspondiente

decía que les proponemos que en el estudio técnico a realizar se tengan en cuenta las siguientes actuaciones instalación de regulación semafórica con pulsador de paro proyecto y colocación

todos conocemos es decir qué le ha respondido el departamento a la junta administrativa de arkaute durante este tiempo yo le pido

de lo posible de la medida de lo posible preste atención

en relación con el estudio y en relación sobre todo con las medidas concretas que pueda sugerir su departamento puede llevarlos a cabo pero sí que pueda sugerir

con la diputación foral de álava con la propia junta administrativa yo creo que eso será bueno ese enlace de negociaciones y de respuestas

de peligro que se han analizado hay animales también cruzando la carretera está cerca de salburua o sea que yo creo que necesita un cuidado especial

estoy de acuerdo con lo que usted ha planteado no corresponde al

de gasteiz y al departamento de infraestructuras viarias y movilidad de la diputación evaluar las medidas que se adoptaron en su día y analizar si hay necesidad de adoptar otras medidas que se traslade ese análisis a la dirección de tráfico en las reuniones que periódicamente se mantienen entre la dirección de tráfico y las diputaciones forales y en concreto la diputación foral de álava por nuestra

analizaremos esas propuestas las propuestas que traslade la diputación analizaremos valoraremos las medidas y lógicamente en la parte que nos pueda competer y que se consideren oportunas se trasladarán y se implantarán esas medidas

como todas las carreteras lo que buscamos es la seguridad vial por tanto esas reuniones periódicas que se hacen con las diputaciones

son para eso precisamente para valorar las medidas a adoptar para valorar la problemática específica que hay por tanto

en esa reunión analizaremos lo que la diputación tenga a bien trasladar después de esa valoración y propuesta de medidas que realice no le quepa ninguna duda

buenos días señora consejera le voy a interpelar hoy sobre la empresa general electric

la historia que le voy a contar podría ser la de cualquier empresa de este país la de muchas empresas

tenemos en general electric una empresa con beneficios hasta hace poco

una empresa con unos costes salariales estables y competitivos una empresa con planes de expansión hasta el punto de que inaugura una nueva planta en abril de dos mil quince y de repente de la noche a la mañana

en unos meses la palabra es deslocalización el motivo es la deslocalización esto es una deslocalización de manual alstom y general electric son empresas competidoras general electric en la economía capitalista el pez grande se como al chico general electric se queda con el negocio y los clientes

a países más baratos como china e india la pregunta es qué podemos hacer al respecto y quienes ganan y quienes pierden los que pierden están ahí arriba

una empresa competitiva una empresa no solo viable sino rentable y a día de hoy o de mañana no vamos a tener nada claro para que se produzca el cierre de la planta tiene que haber un ere

cuando le he preguntado qué podemos hacer

eso qué podemos hacer qué pueden hacer ustedes qué puede hacer toda esta sociedad para impedir esto

para poder cerrarse la planta como digo tiene que haber unas razones económicas productivas y organizativas

la empresa organiza cuando digo la empresa multinacional organiza esto de manera

qué hace la empresa en primer lugar disminuir los pedidos de la fábrica

decide que proyectos ya programados y con carga de trabajo en la empresa se lleven a otras plantas por un lado

no oferta en proyectos donde la planta de bilbao era competitiva no los oferta no vaya a ser que se los den y por otro lado

la carga de trabajo a la competencia con tal de no fabricar en la planta de ortuella de esa manera justifican que no hay trabajo como no hay trabajo se incrementan los costes salariales lo que hacen es la tasa horaria es decir el coste laboral de la fábrica

apenas con una subida de un uno por ciento anual en el año dos mil diecisiete sube un cincuenta y seis por ciento los costes laborales por qué hay más plantilla no cobran más no lo que hacen es establecer una tasa horaria en función de la carga de trabajo de la fábrica como hasta ahora consideraba una carga de trabajo de ciento veinte mil horas anuales y les ha quitado todos los pedidos

en consecuencia se duplica la tasa horaria se duplica los costes laborales de la fábrica

la empresa ha creado el agujero por el que hacer desaparecer la planta de ortuella esto en cuanto a los costes de taller en los costes de ingeniería todavía es más evidente se incrementan los costes en dos mil diecisiete un cuarenta por ciento sin que haya más personal al contrario hay una persona menos en ingeniería

tienen unificados sus gastos a nivel global sin embargo los costes de ingeniería de la planta de ortuella suben un cuarenta por ciento y los de la planta de la india un veinticinco por ciento menos es que son quienes se van a llevar

cuál es el papel del gobierno el gobierno tiene un papel a través de la inspección de trabajo y hay mi interpelación los trabajadores esto se lo veían venir y presentaron un informe a la inspección del trabajo el veinticuatro de junio antes de declararse el ere

no responder no investigar al contrario cuando se filtró a la prensa que el día cinco de julio iba a ver un ere entonces

ya investigaremos pero el papel de la inspección de trabajo clave es fundamental porque el informe de la inspección de trabajo es preceptivo y como ya ha dicho el tribunal supremo en alguna ocasión

haya de juzgar la legalidad de la decisión empresarial de la que se trate de ahí

hay que hacerlo con cuidado con cariño con compromiso con compromiso porque ese informe no puede evaluar solamente

sino material qué dicen esos papeles y tiene que hacer un control

hay ejemplos múltiples de cómo un buen informe de la inspección de trabajo

que presentó dos ere y los dos se lo tumbaron los jueces a través de informes de inspección de trabajo tenemos la deslocalización de zardoya otis también

pero además el ere lleva una fase de consultas una fase de consultas que también lleva un control de legalidad es necesario que la empresa negocie de buena fe y el tribunal superior de justicia de asturias en la deslocalización de tecneco dijo que no era buena fe mantener una posición empresarial inamovible ante el cierre

y tampoco es buena fe vulnerar el derecho de huelga como también se ha hecho en más de un ere y en resumen en resumen la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia dicen que la deslocalización empresarial no es nunca una causa válida para el despido colectivo

que en su momento dijo que la deslocalización no es justificada desde un punto de vista objetivo de la legislación laboral y de responsabilidad social a la que las empresas se deben porque no hay causa económica que ampare la destrucción de empleo cuando la misma solo se basa en la conveniencia empresarial

estoy leyendo la sentencia del tribunal superior de justicia de madrid pero hay otra del tribunal superior de justicia de cataluña que dice la mera deslocalización no puede ser amparada por este precepto cuando responde solo a la subjetiva determinación de la dirección del grupo

y la directiva noventa y ocho barra cincuenta y nueve de la unión europea es decir la deslocalización empresarial no está en ningún caso amparada por la ley ni justificada y cuando se presenta un ere de extinción que está basado en un ejemplo de manual como es este

fundamental que la inspección de trabajo haga bien su trabajo valga la redundancia

un informe de valor probatorio que tumbe este ere de extinción porque la única salida que le queda a esta empresa que le queda a este comité de empresa que le queda a esta plantilla

que vive de que esta empresa exista es que la administración haga uno con sus demandas que vayamos todos a bloque en esta cuestión porque de lo contrario no se puede hacer frente a un

se cerrarán las plantas de aquellos territorios donde se pongan menos pegas al cierre y por eso es fundamental la labor que tiene que hacer su departamento que tiene que hacer la inspección de trabajo en esta cuestión por eso me gustaría saber hoy cuál es el grado de compromiso de su departamento para garantizar

porque existen pruebas que demuestran que es fraudulento se va a tumbar sin necesidad de llegar

a vías judiciales que en un momento dado puedan ser tardías porque ya sabe usted que cuando una empresa se cierra es muy difícil reabrirla y mucho más si está en manos de una multinacional

interpela sobre los planes del departamento de trabajo y justicia para evitar que se produzca una actuación fraudulenta en el procedimiento de tramitación del expediente de regulación de empleo

con toda mi consideración señoría le tengo que responder que el departamento

como lo hace ante cualquier otra circunstancia similar cumpliendo la ley cumpliendo la ley para impedir que se produzca fraude alguno

de un expediente de regulación de empleo le recuerdo que como bien sabe la reforma laboral implantada por el real decreto ley de febrero del dos mil doce cambios importantes en el artículo cincuenta y uno del estatuto de los trabajadores limitando la actuación de la autoridad laboral en esta materia

de los procedimientos de expediente de regulación de empleo la principal modificación clave para contestar a su interpelación

la autorización de la autoridad laboral para llevar a cabo el despido colectivo salvo en los supuestos de fuerza mayor como causa de la extinción esta autorización constituía la llave

se llevarán a cabo procesos de negociación que minimizaran las consecuencias negativas de estos procesos por lo que atañe a las competencias asignadas

voy a describirle someramente cuáles son las acciones y funciones de la inspección de trabajo en estos casos el marco que regula esta actuación

por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo de suspensión de contratos

concretamente el artículo once del real decreto es el que se refiere al informe preceptivo

la autoridad laboral es quien recibe la comunicación de la decisión empresarial colectivo junto con la documentación requerida posteriormente la autoridad laboral la remite a la inspección de trabajo y a partir de ese momento

y digo en ese momento en el plazo improrrogable de quince días desde la notificación a la autoridad laboral

y queda incorporado al procedimiento el informe debe dar cuenta

concretamente reflejara los siguientes apartados constatara que la documentación presentada por el empresario en relación a las causas

es decir si se produce por causas económicas por causas técnicas organizativas o de producción también debe incluir la constatación de que se ha aportado la documentación común a todas las variantes del procedimiento el informe hará énfasis en verificar que los criterios para la designación de los trabajadores y las trabajadoras afectadas por el despido no resultan discriminatorios por razones de edad discapacidad sexo origen estado civil condición social religión ideas políticas orientación sexual afiliación sindical y demás supuestos contemplados

otro apartado importante del informe es la comprobación por parte de la inspección de trabajo y seguridad social

el objetivo del periodo de consultas es decir que se haya tratado de llegar a un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores que se hayan estudiado las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos es una materia que debe incluirse

como bien sabe usted señor becerra en todo expediente de despido colectivo

sociales de acompañamiento y una valoración de las mismas estará incluida en el informe al que me estoy refiriendo por otra parte si el despido colectivo

procedimiento debe incluirse un plan de recolocación externa para los trabajadores y trabajadoras afectadas el informe de la inspección de trabajo y seguridad social comprobara y dará fe de que es

en definitiva un aspecto fundamental de la actuación de la inspección de trabajo es velar por que no se cometa fraude dolo coacción

en la conclusión del acuerdo adoptado en el periodo de consultas por tanto señoría existe una normativa que trata de evitar cualquier fraude o intento de fraude es una normativa garantista

son los trabajadores y trabajadoras afectados por un expediente de regulación de empleo es posible que tanto usted como yo quisiéramos que fuera otra la normativa pero tengo que decirle que el departamento de trabajo y justicia y la inspección de trabajo le corresponde hacer cumplir

hasta aquí señor becerra la explicación de las competencias asumidas por cada parte y la responsabilidad que corresponde al departamento que dirijo pasando a la situación concreta de la planta general electric de ortuella señalar que la empresa presento el dieciséis de octubre expediente de despido colectivo

a ciento cuarenta y cinco trabajadores de los ciento treinta y siete

entre los afectados hay doce con más de cincuenta y cinco años para los que la empresa ha suscrito un convenio especial con la seguridad social

y repito según la documentación presentada por la misma es económica volviendo a nuestro procedimiento se ha iniciado un periodo de consultas con los trabajadores

dieciséis debido a las circunstancias que le he mencionado anteriormente el departamento de trabajo y justicia con el máximo respeto a la autonomía de las partes y según el marco de las relaciones laborales que rigen nuestro sistema solo podemos a la empresa general electric y a los representantes de los trabajadores a que lleguen a un acuerdo acuerdo que debiera tener como objetivo

del mayor número posible de empleos incluso al mantenimiento

posteriormente se elaborará el informe de inspección de trabajo en los términos

de octubre por mi parte estoy totalmente segura de que dicho informe contendrá

para concluir le reitero en este caso que no son necesarias medidas extraordinarias que sumar a lo ya prescrito tenga la seguridad señoría

será identificado y denunciado por la inspección de trabajo y tenga la seguridad señor becerra de que cualquier vulneración

señora consejera me habla usted de las circunstancias en las que se tiene que mover a día de hoy la inspección de trabajo son circunstancias de todos y todas conocidas me habla usted de un procedimiento y me habla de un plan de recolocación

el acuerdo sea que la planta siga aquí y siga abierta y siga siendo

como lo es ahora me habla usted de que la empresa

en dos mil quince la empresa vendió por valor de veintitrés millónes

nadie en su sano juicio entiende que para vender veintitrés millónes se compren cuarenta y dos excepto que lo que se quiera es tener pérdidas que es lo que consiguen

esas son las causas económicas que está alegando a día de hoy la empresa fraudulentas fraudulentas

a quienes aprovecho para saludar y que han estado con todos los grupos de esta cámara porque están lógicamente preocupados presentaron en junio

de este fraude y la inspección de trabajo no quiso investigar no quiso investigar y ahora cuando se presenta el ere en octubre

qué va a hacer la inspección de trabajo en quince días que no haya hecho en tres meses cómo va a ayudar a la plantilla a desvelar

usted es consejera y por lo tanto tiene una posición política mire cuando la consejera tapia se enteró de esta cuestión declaró a la prensa que

les ha transmitido la necesidad de una reestructuración tras haberles transmitido hace tiempo que la planta no estaba respondiendo a las expectativas previas

ellos hicieron esta apuesta estoy leyendo entrecomillado y ellos hicieron esta apuesta pero el mercado quizás no ha respondido a las expectativas

porque la consejera tapia cree en un modelo económico neoliberal pero usted

o dice serlo y por lo tanto su posición no puede ser la misma que la de la consejera tapia no puede ser la misma usted es socialista usted tiene que mostrar desde su puesto desde su puesto de dirección un compromiso con la plantilla

y un compromiso con la margen izquierda y con la zona minera que siempre la tienen en la boca

no puede limitarse a eso porque el fraude es evidente

no se puede limitar a eso señora consejera porque hay muchas familias muchas familias angustiadas por esta situación máxime teniendo en cuenta y lo vuelvo a recalcar que esta es una empresa

moderna sostenible es una empresa que se va a deslocalizar sin ninguna razón real para deslocalizarse y eso no se puede quedar en la lectura de un mero procedimiento administrativo y no se puede sustanciar en un informe de la inspección de trabajo evacuado en quince días deprisa y corriendo comprobando que la empresa ha entregado todos los papeles no se puede quedar en eso porque si no tenemos un compromiso como país como país donde

y la administración el gobierno vayamos todos a una estos gigantes nos barren del mapa hoy es general electric y mañana será otra empresa

y siempre siempre o casi siempre con actuaciones fraudulentas de las multinacionales que para eso tienen bufetes de abogados y para eso tienen

pensando en cómo cerrar plantas en cómo llevarse la producción para incrementar sus beneficios y eso no es lo que queremos en esta sociedad entiendo que no es lo que quiere usted como socialista y desde luego no es lo que quiere nuestro grupo nada más muchas gracias

señor becerra en mi primera intervención le he hecho una exposición del procedimiento porque usted me interpela como departamento de trabajo y justicia y me pregunta

mi departamento como ha dicho usted a través de la inspección de trabajo tiene que actuar pero no quiero que le quede la sensación de que nuestra intervención es simplemente de gestión pues entiendo con usted de que

social y humano que requieren de una respuesta política acorde con este problema por una parte le diré que no me siento identificada en absoluto con la reforma laboral que impuso el gobierno del partido popular mediante el real decreto de dos mil doce

de jornada no me parece que la ampliación de las causas objetivas por las que se pueden solicitar las medidas de despido sean las más acordes con una visión social progresista y de defensa de los derechos de los trabajadores

la reforma laboral implantó un despido más barato con menos requisitos y con más posibilidades de cambiar las condiciones laborales establecidas para los trabajadores y trabajadoras

aquella reforma supuso un dura golpe para la negociación colectiva pues dio

de ámbito superior hizo lo mismo con respecto a la tramitación de los intervinientes en el procedimiento de un expediente de regulación de empleo el departamento de trabajo y justicia junto con todo el gobierno vasco estamos

en euskadi sobre todo a partir del acuerdo al que llegaron los agentes sociales

en enero de este año apostamos por el diálogo social y mi apuesta siempre es la negociación entre las parte y ello requiere un equilibrio que es necesario

mediante el impulso de los convenios colectivos pero quiero expresarle señor becerra mi convencimiento de que las empresas que se ubican en nuestro país

de arraigo y con proyectos que reporten beneficios para el conjunto de la sociedad proyectos que no busquen el enriquecimiento rápido y la desubicación cuando no se cumplen las expectativas estimadas a corto plazo el gobierno vasco apuesta por las empresas que se implican en nuestro entramado socioeconómico y puedo asegurarle que son muchas la inmensa mayoría de nuestras empresas colaboran y enriquece nuestra comunidad

trabajo y justicia va a cumplir lo establecido en las normas pero más allá de lo que digan estas vamos a ejercer siempre que podamos la labor de mediación que también nos incumbe en este sentido tenga la seguridad de que atenderemos cuantas propuestas

cumpliendo con esta voluntad y con independencia del informe que está elaborando la inspección de trabajo el pasado día treinta y uno de octubre el departamento de trabajo y justicia se reunió con una de las organizaciones sindicales representativas electric que solicitó un encuentro el viceconsejero de trabajo y seguridad social y la directora de trabajo se reunieron con los representantes sindicales para analizar las posibilidades de encontrar soluciones alternativas al expediente de regulación de empleo presentado tenga la seguridad señor becerra de que seguimos trabajando en esta línea de atender a los sindicatos y a los comités de empresa espero

sobre las garantías que existen y sobre la actitud que mantiene el departamento de trabajo y justicia besterik ez eskerrik asko eskerrik asko san josé

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on denoi desde eh bildu se nos interpela en relación a las medidas que se adoptarán para responder adecuadamente a las insuficientes condiciones actuales que consideran rodean a las obras públicas de la comunidad autónoma vasca en la interpelación

consideraciones sobre denuncias por parte de organizaciones sindicales accidentes laborales y calidad de los edificios

quiero manifestarle que en el último aspecto

no está entre las actuaciones del departamento de trabajo y justicia esta competencia pero de todas formas señora ubera

ejecutada por el gobierno vasco por los diferentes departamentos del gobierno vasco se rige por las condiciones que se especifican

ley que como usted sabe se ha modificado recientemente para incorporar preceptos que se contienen en las directivas del parlamento europeo y del consejo normas que inciden en la mayor transparencia de la contratación pública y en conseguir una mejor relación calidad precio es en este segundo objetivo donde lejos de suponer un criterio economicista se define en la propia exposición de motivos y cito textualmente

de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras suministros y servicios de gran calidad mediante la inclusión de aspectos

e innovadores vinculados al objeto del contrato por otra parte sabe usted señoría que en nuestra comunidad autónoma el cumplimiento de las obligaciones laborales en la contratación pública debe ser verificada por los poderes públicos tal y como dicta la ley tres barra dos mil dieciséis de siete de abril para la inclusión de determinadas cláusulas sociales

pero vayamos a los temas en que su interpelación se relacionan con las competencias que están atribuidas al departamento de trabajo y justicia me voy a remontar a años atrás para explicarle que desde el gobierno siempre ha habido una disposición con respecto a la relación que debe existir entre la salud laboral y la obra pública pero para ir a lo concreto y para definir posteriormente lo que en la actualidad y desde hace años

me ceñiré al acuerdo existente entre el gobierno vasco y las diputaciones forales el dos de junio del dos mil diez se firma un protocolo de actuación

por las administraciones públicas del país vasco lo suscribieron por parte del gobierno vasco el consejero de vivienda obras públicas y transportes iñaki arriola el consejero de industria innovación

por las diputaciones el diputado de obras públicas y transportes de álava

y en este protocolo la primera manifestación que se realiza es la siguiente la prevención de riesgos laborales es uno de los ejes de la política de las administraciones públicas

hay que explicitar también que antes de la adopción del protocolo

de dos mil diez en el plan estratégico dos mil siete dos mil diez de seguridad y salud laboral del país vasco aprobado por el consejo de gobierno vasco de tres de julio del dos mil siete se incluía entre sus objetivos estratégicos la necesidad de coordinación institucional en materia de seguridad y salud laboral

esta actuación preventiva de carácter general y otra específica para

en cada uno de los tres territorios integradas por técnicos de todas las administraciones públicas implicadas y esta es la fórmula con la que seguimos trabajando hoy a través de las tres comisiones territoriales y actuando como secretario secretarias los titulares de las delegaciones

participando un técnico de osalan como representante del departamento de trabajo y justicia un técnico del departamento afectado la inspección de trabajo y seguridad social y un representante de la diputación foral del territorio en el que promueve la obra y con esto creo señora ubera que doy respuesta a lo que para usted

es la principal preocupación la preservación de la salud y la seguridad laboral de las personas que trabajan en este caso

no puede usted decir que el gobierno vasco mira para otro lado le aseguro que no ni el gobierno vasco ni el resto de administraciones

corresponde y demostramos hacerlo sino que habla también de un incumplimiento de convenios colectivos y de las dificultades de seguimiento en la cadena de subcontratación permíteme indicarle que desde el departamento de trabajo y justicia y en relación a los posibles incumplimientos laborales convenios colectivos

de contratación etcétera se actúa como usted ha señalado desde la inspección de trabajo y tampoco la inspección de trabajo mira para otro lado

entendemos que desde la inspección de trabajo no debe hacer distinciones a ningún colectivo bien desarrolle su trabajo en la obra pública bien lo haga en cualquier otro sector no obstante en actuaciones planificadas

un inspector o una inspectora tienen asignadas

a este tipo de obras para verificar que se respetan las condiciones de seguridad y salud y se cumplen con las obligaciones empresariales en materia de relaciones labores salarios jornadas

pero además usted sabe cuál es mi posición sobre la precariedad laboral y en este sentido quiero recordarle la campaña específica que viene desarrollando la inspección de trabajo sobre el trabajo temporal y los contratos a tiempo

también conoce mis continuas demandas para la negociación colectiva

y alcancemos una negociación colectiva que todos creímos vislumbrar

interprofesional de diecisiete de enero firmado por la representación empresarial y todas las organizaciones sindicales

compete al departamento de trabajo y justicia vamos a incrementarlos

al menos hasta dos mil veintitrés está planificada más obra pública y nosotros

para que los trabajadores y trabajadoras que participan en las mismas lo hagan con la seguridad y en las mejores condiciones con empleos de calidad

señora ubera ya le he explicado cuales son las competencias que corresponden a este departamento de trabajo y justicia y me voy a referir exclusivamente a ellas

más y asumo el reto y lo hago extensible a todos los agentes sociales y a todas las organizaciones sociales porque

una actitud proactiva en esta materia y ello conlleva que no elija únicamente un camino de denuncia pública como hacen otros

pido que se trabaje conjuntamente en los órganos de participación institucional que el gobierno vasco y mi departamento más en concreto dispone para la participación de todos y todas

el consejo vasco de formación profesional la mesa de diálogo social y órganos bipartitos como el consejo de relaciones laborales y el consejo económico y social y todos ellos son instrumentos que deben servir

algo que decir para mejorar la salud y seguridad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras las condiciones laborales y las condiciones de subcontratación reconociendo no obstante que la negociación colectiva corresponde a los representantes de los trabajadores y a los empresarios y sindicatos señora ubera no considera

la oportunidad de participar en esos órganos no cree que podemos mejorar gracias a la participación colaboración y compromiso de todos los que tengamos algo que decir y participar en ellos uno de los

vasca de seguridad y salud en el trabajo se refiere a las administraciones públicas y dentro de este eje

especifica que la promoción para que los pliegos de condiciones de los contratos con la administración pública contemplen compromisos concretos de seguridad y salud laborales justificados desde la óptica de la prevención de las condiciones de trabajo tales como jornada horarios y periodos de descanso también se contempla

cumpliendo la integración de la prevención de las empresas que habitualmente actúan con contratas o subcontratas

prestan sus servicios en empresas clientes es nuestra obligación y trabajamos todos los días para mejorar y para dar

le voy a dar algunos datos de actuaciones de las comisiones territoriales esas que dice usted que no funcionan y que no tienen actuación como

le manifiesto que normalmente las visitas se realizan conjuntamente entre osalan y la inspección de trabajo

es en este territorio histórico de gipuzkoa donde la comisión

ha celebrado reuniones el tres de marzo el veintitrés de junio

a las obras del tren de alta velocidad se han realizado nueve visitas a las de promoción de viviendas en txomin enea han sido tres otras tres al cerro de san bartolomé otras dos a la estación de loiola dos más al tramo antzuola bergara de la gi seiscientos treinta y dos y dos más a las obras de la incineradora de zubieta tanto las obras

y para este mes de noviembre están previstas nuevas actuaciones

quiero terminar mi intervención con tres compromisos primero reunir a la comisión interinstitucional de la obra pública para estudiar medidas adicionales ante el incremento de obras públicas que sin duda se ejecutaran en los próximos años

antes continuar implicando a los agentes sociales en las acciones que venimos desarrollando y que se enmarcan dentro de la estrategia vasca de seguridad y salud laborales

implicando a todas las partes y las correspondientes comisiones tripartitas que cuentan con representantes de la administración trabajadores y empresarios

las actuaciones de la inspección de trabajo para velar por el cumplimiento de la normativa laboral y los convenios que corresponden espero haber respondido a sus inquietudes eskerrik asko